como todos sabemos el dieciocho de julio mil novecientos treinta y seis

esta acción delictiva y violenta dio lugar a una guerra civil que duró casi tres años la guerra ocasionó un millón de muertos e innumerables represaliados presos unos los que ganaron honraron a sus muertos compensaron a sus víctimas

el golpe de estado instauraron un régimen dictatorial que continuó produciendo víctimas

por defender la democracia y siguió haciéndolo contra toda persona que se opuso a su ilegítimo régimen esta represión

muchos de los cuales no pudieron conocer la reinstauración de la democracia se produjeron pues

rotas de injusticias no reparadas de necesidad de recuperar memorias individuales

esta necesidad de realizar un reconocimiento rehabilitar y compensar

tuvo que convivir con la voluntad de reconciliación pero la concordia

se puede decir posiblemente con razón que en aras de facilitar la convivencia se sumió en desamparo a las víctimas también se dirá que se dilató mucho en el tiempo su reconocimiento

los socialistas independientemente de la intensidad que se haya aplicado a la recuperación de la memoria no hemos renunciado nunca a que se conozca toda la verdad de lo sucedido de que se alcance una reparación digna y de que se establezcan garantías de no repetición somos conscientes de que uno de los déficit más sangrantes de todo esto ha sido la impunidad

por eso porque estamos en contra de toda impunidad apoyamos la iniciativa de la magistrada

maría servini de cubría como apoyamos en su día la del jurista español baltasar garzón consideramos

para hacer justicia debe ser apoyada y reclamamos al gobierno de españa que facilite su labor y no entorpezca las diligencias de la misma creemos

independientemente de que hayamos firmado o no la pnl por lo que

la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo

las instituciones españolas ni investigan ni cooperan con las investigaciones llevadas a cabo por otros países y los tres poderes del estado están actuando

las actuales instituciones son responsables de que a las víctimas de la represión franquista no se les diera pronta y efectiva

es por ello que las instituciones actuales tienen la obligación política moral y jurídica de asegurar que se realicen todas las investigaciones pertinentes para depurar responsabilidades denunciar a los perpetradores ante los tribunales asegurar que se adopten todo tipo de sanciones y reparar a las víctimas o a sus familiares sea donde sea

estas investigaciones y estas depuraciones que estas víctimas que han luchado

no vuelvan a encontrarse jamás desprovistas del necesario calor social político e institucional besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

erreparazioa eta biekin lotuta justiziarena pero la sentencia del tribunal supremo

declara que los jueces españoles no deben investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo y lo hace en base a varios argumentos

en la ley de amnistía y en la ley de memoria histórica cómo es posible que los tribunales del estado no sean competentes para investigar los crímenes de la dictadura española

cuando los casos de ambos son delitos derecho internacional y por ello imprescriptibles

como las desapariciones forzadas son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos

el estado español que las desapariciones forzadas deben ser investigadas hasta conocer la suerte de la víctima entendemos que un estado tal y como hemos dicho antes

máxime cuando el estado en cuestión ha firmado los citados tratados

su cumplimiento tanto en el caso de españa la constitución española en el artículo diez y en el artículo

se interpretarán de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por españa

que las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados internacionales suscritos por españa

el estado español no debe escudarse en la ley de amnistía de mil novecientos setenta y siete para evitar investigar los crímenes del franquismo y mucho menos

que mediante el principio de jurisdicción universal aplicable en este tipo de delitos

estos crímenes por todo ello el grupo nacionalistas vascos apoya la querella cuatro mil quinientos noventa y uno barra diez contra los responsables de la conculcación de derechos humanos durante el franquismo

el derecho a la verdad la justicia y la reparación abogamos para que también las víctimas del franquismo vean reconocidos estos derechos como garantía de no repetición

como derecho individual a la verdad ya que hoy siguen vivas muchas personas que fueran víctimas del franquismo también como derecho colectivo porque la memoria
lo vivido y sufrido por muchos vascos forma parte del patrimonio de nuestro pueblo mila esker eskerrik asko

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari miembros del gobierno señoras y señores parlamentarios

en relación con esta proposición no de ley que presenta bildu junto con el grupo socialistas vascos y el grupo nacionalistas debemos de manifestar que hemos realizado

y que nuestra posición será de apoyo a esa referencia y no a la proposición no de ley que suscriben esos grupos debemos decir una vez más

en la constancia de los pronunciamientos parlamentarios que mi grupo

de mil novecientos treinta y seis y el régimen que les siguió denuncia y condena las atrocidades y los crímenes que se cometieron en la guerra civil por ambos bandos y los que se cometieron después de la guerra por quienes sostenían el régimen dictatorial las detenciones los asesinatos las persecuciones y la falta de libertad

se cometieron en españa y hemos querido enmarcar

en nuestra enmienda y en los pronunciamientos que recordamos y reiteramos de la comisión constitucional de veinte de noviembre de dos mil dos y del pleno del parlamento vasco de siete de marzo de dos mil uno ambos pronunciamientos son exigentes claros

y se unen a los argumentos que mi grupo defiende

que sirvió a partir de la transición para superar la etapa franquista para enterrar la división para disolver los bandos

esta legislación española que arrancó en la ley de amnistía de mil novecientos setenta y siete a la que siguió la constitución española

y con posterioridad más de veinte leyes y otros instrumentos jurídicos que fueron relativos a pensiones

indemnizaciones rehabilitaciones aplicación en definitiva de una justicia necesaria de una justicia merecida

en dos mil siete se aprobó la llamada ley de memoria histórica y a su amparo no solo se han mantenido muchas de esas medidas sino que se han incrementado y

en sus fundamentos de derecho la ley cuarenta y seis barra mil novecientos setenta y siete de amnistía fue consecuencia de una clara y patente

ideológicamente contrarias al franquismo fue una reivindicación considerada necesaria e indispensable dentro de la operación llevada a cabo para desmontar

pues la denominada transición española exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo en sus posturas tal orientación a la reconciliación nacional en la que se buscó que no hubiera dos españas enfrentadas se consiguió de muy diversas y diferentes medidas una de ellas fue

de amnistía la idea que presidió la transición fue el abandono pacífico del franquismo para acoger un estado social y democrático de derecho

del primer apartado del primer artículo de nuestra constitución de mil novecientos setenta y ocho como dice también esa sentencia del tribunal supremo

esencial insustituible y necesario para superar el franquismo y lo que este suponía precisamente porque la transición fue voluntad

ningún tribunal en modo alguno puede cuestionar la legitimidad de tal proceso se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería en exclusiva al parlamento español y no a ningún tribunal

mi grupo comparte esta posición y las consideraciones que realiza el tribunal supremo y está claro que lo que pretende esta proposición no de ley es directamente un apoyo a una querella que mi grupo considera

se escapa del marco jurídico y político y del penal en relación con las pretensiones reclamadas

en las querellas aludidas y tras la posición del tribunal

se ha realizado posteriormente un peregrinaje jurídico a la busca de un tribunal que en argentina ha querido tomar juego en la causa

veremos lo que ocurre pero no estamos dispuestos a apoyar ese trámite en el juzgado número uno de buenos aires con la magistrada servini de cubría a la cabeza y no estamos dispuestos a que se vulnere

y sobre todo la seguridad jurídica en este caso recientemente en el congreso de lo diputados se planteó la modificación de la ley de amnistía

y no prosperó no prosperó la modificación de esa ley del setenta y siete incluso el partido nacionalista vasco

votó en contra o sea que en definitiva es un poco contradictorio con lo que hoy traemos a colación nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad la enmienda de totalidad es clara es inequívoca

forma parte del pronunciamiento de la comisión constitucional del congreso en dos mil dos el punto número dos forma parte de una importante declaración que este parlamento hizo en dos mil uno

no solamente esos dos primeros apartados de las respectivas declaraciones del congreso y del parlamento vasco sino que todas ellas

en lo que nosotros pudiéramos pensar que es lo necesario a la hora de aprobar una declaración de estas características y el punto número cuatro de nuestra enmienda de totalidad pues se reafirma en los principios inspirados en la transición política

setenta y siete de quince de octubre de amnistía como la constitución

planteamientos inequívocos en los que se fundamenta y se basa la posición del partido y del grupo popular

nosotros hemos presentado esa enmienda de totalidad vuelvo a decir pero queremos decir que algunas de los posicionamientos de la proposición no de ley que presenta bildu

y olvidadizos el punto tercero de la

el papel jugado por buena parte de las oligarquías agrarias financieras industriales y la jerarquía de la iglesia con su apoyo al golpismo primero y al régimen fascista posterior y falta el reconocimiento

que desde sus puestos profesionales sufrieron también en el país vasco aquí y fueron asesinados fusilados en paseos por tener una fábrica por trabajar en un determinado puesto

asesinados y masacrados eso falta

hay que abordar y hay que abarcar la verdad en su integridad no se puede decir que toda la jerarquía de la iglesia justificaba el franquismo y esas

riguroso en el país vasco muchos industriales muchos empresarios y muchos religiosos sufrieron mucho por culpa del bando contrario precisamente al franquista y eso también hay que reconocerlo

y no me digan que el punto cuatro no tiene ya un recorrido claro ese camino que reclama el punto cuatro de la

y garantía de no repetición han formado parte del concierto legislativo y normativo que empezó con la ley de amnistía seguido con la constitución con más de veinte leyes

ese punto número cuatro no hay que rescribir la historia la historia está escrita

y nuestro régimen democrático y de libertades vuelvo a decir la historia está escrita la historia condena al franquismo y nuestro régimen democrático y de libertades es la garantía de que no algo igual yo voy a acabar acabo volviendo a lo dicho en las intervenciones parlamentarias de mil novecientos setenta y siete en relación con la aprobación de la ley de amnistía que un parlamentario dijo la amnistía era simplemente el olvido la amnistía de todos

si nosotros somos los representantes y el cauce de esta sociedad debemos ser también el ejemplo a la misma con nuestro mutuo olvido

que esa concepción del olvido vaya ensanchándose vaya haciéndose cuerpo y corazón porque es la única manera de que podamos darnos la mano

y concluyó su intervención diciendo señorías la amnistía es un camino de reconciliación pero es también un camino de credibilidad

decir es que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi han decidido firmar una iniciativa parlamentaria para denunciar al parecer no para condenar determinados crímenes y hechos violentos y violaciones de derechos humanos ocurridos hace décadas

formación política que sigue sin condenar los crímenes cometidos aquí hasta hace cuatro días por la banda terrorista eta obviamente nosotros

mucho menos firmaríamos iniciativas de este tipo no podríamos en ningún caso denunciar crímenes cometidos hace décadas de la mano de una formación política que no condena los crímenes cometidos aquí hasta ayer mismo sin embargo el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

han decidido hacerlo y a nosotros nos parece un gravísimo error nosotros

sino que condenamos contundentemente otra vez porque otras veces ya se ha hecho la sublevación militar fascista del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y la posterior guerra y la dictadura franquista y la represión franquista y las vulneraciones de derechos humanos cometidas y los crímenes

y la supresión de las libertades públicas y el papel jugado y el apoyo al franquismo por parte

y española al fin al cabo bien sabemos que la guerra civil no fue una guerra de españoles contra vascos ni la dictadura una dictadura española contra euskadi como algunos pretenden

sino un enfrentamiento de dictadores contra demócratas todo esto denunciamos y condenamos y todos los crímenes cometidos durante ese periodo

no hay nada del franquismo que pueda salvarse salvo una cosa

así lo expresa nuestra enmienda con la que obviamente nos solidarizamos con todas las víctimas que sufrieron las consecuencias de la violencia originada por la sublevación del dieciocho de julio del mil novecientos treinta y seis contra el legítimo gobierno republicano

dictadura franquista por lo demás y esto es lo que nos distancia de la propuesta original nosotros mostramos nuestro inequívoco respaldo al proceso de la transición democrática española proceso que logró cerrar

un periodo democrático sin parangón en la historia de españa un periodo que asentó las bases de la convivencia y que permitió un desarrollo económico y social sin precedentes en nuestra historia o tal como dice el punto cuatro de la enmienda del partido popular que nosotros

nos reafirmamos en los principios inspirados de la transición política y su materialización legislativa tanto en la ley de amnistía como en la constitución española la ley de amnistía se dicta inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas

mil novecientos setenta y siete y por tanto se debe al primer congreso de los diputados de la democracia ocupado también en ese momento en la elaboración de la constitución

la amnistía es una decisión legislativa de carácter general que extingue la responsabilidad penal y sus efectos la ley de amnistía afectó a franquistas y antifranquistas y su objetivo era eliminar algunos efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar la consolidación

democracia la ley otorgaba amnistía total para todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y el uno de diciembre de mil novecientos setenta y seis

iniciativa firmada por eh bildu partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi de esta iniciativa que pretende denunciar al franquismo treinta y ocho años después de muerto franco

para que no vuelvan a repetirse crímenes tan despreciables en nuestra opinión son la transición democrática y la constitución española la mejor garantía

se abrió un periodo democrático sin parangón en la historia de españa solo enturbiado

y sus servicios auxiliares el último reducto del franquismo todavía vivo en fin todas estas razones así como la ley de memoria histórica hoy vigente son las que nos han llevado a presentar nuestra enmienda de totalidad defenderla y llegado el caso votarla

de un artículo de opinión publicado el pasado día treinta de mayo cuyo autor es

dos frases que creo que dicen mucho y que nosotros compartimos el neoantifranquismo no se opone al franquismo que desapareció hace tiempo sino que cuestiona las bases consensuadas de la democracia nacida en la transición y termina diciendo ojalá el antifranquismo

otro gallo hubiera cantado gracias eskerrik asko

tanto al señor barrio como al señor maneiro

el defender y el exigir que todos respetemos el estado de derecho

el estado de derecho y exigimos que todo el mundo lo respete les diría que por esta misma razón también estamos de acuerdo con

y uno de esos avances es que en casos de lesa humanidad de crímenes de lesa humanidad que

y que por lo tanto no deben quedar impunes se aplique el principio de

esto es lo que aquí se está apoyando apoyar que una jueza argentina en aplicación de este derecho universal

para procesar los crímenes que aquí se cometieron de la guerra y la posterior dictadura es eso lo que se está apoyando y yo creo que revolver o hacer lecturas torticeras de esto

a ningún punto de encuentro yo creo que en esto podíamos estar

no solamente de condenar lo que ocurrió sino de respetar los principios universales por los que un juez una juez en este caso

con algo que ocurrió en españa lo mismo que un juez español pudo abrir procedimientos contra un dictador chileno en su momento es equiparar en este caso

ajustarse a lo que la jurisdicción internacional dice es esto si se quiere pensar podemos sobre si se ha llegado o no se ha llegado al suficiente consenso en españa nosotros defendemos que efectivamente

desde ese posicionamiento y de la exigencia del respeto a ese estado de derecho aquí en españa también respetamos esta iniciativa basada como digo

de jurisdicción internacional muchas gracias eskerrik asko

hona ekarri nahi diguna se hace reivindicación del olvido tal vez mediante palabras de otros o invocando otros discursos

es el discurso del olvido bendita modélica y pacífica transición aquella que intentó

realmente se quiso hacer aquello sin depuración de responsabilidades

en gasteiz al pueblo trabajador de gasteiz y a la masacre sufrida el tres

con sus responsables unos muriendo en la más completa impunidad y otros aún vivos

de poder pp y upyd hoy lo que nos traen es una línea de amparo y de cobijo a criminales

justiziari el ocho de mayo tres víctimas del franquismo estaban a punto de prestar declaración por videoconferencia desde el consulado argentino en madrid

tras una espera de hora y media se les comunicó que se había suspendido la toma de declaración la razón

había manifestado su malestar por el procedimiento se puede hablar de respeto a las normas y reglas del juego también aquellas internacionales se puede hablar del respeto a la justicia también a la universal o realmente los enmendantes

que viene del ámbito internacional una de las víctimas que estaba a punto de declarar decía esto es un maltrato otro más es realmente eso lo que vemos lo que traemos hoy esta iniciativa la trajo la

que quería reivindicar y que pedía a las instituciones el apoyo para esa reivindicación de justicia de memoria y de verdad usted ridiculizaba el peregrinaje que habían tenido que hacer y que les había llevado a recalar

le da igual señor carmelo barrio tal vez le dé exactamente igual pero ese peregrinaje es el que nosotros ponemos en valor

queremos poner en valor porque esta gente precisamente lo que ha tenido que hacer es buscar en argentina lo que las instituciones españoles no les dan lo que las instituciones españolas la ley de mil novecientos setenta y siete usted dice que fue una ley de amnistía porque los antifascistas estaban en prisión cierto sin ninguna tutela judicial pero los fascistas fueron los que nunca siquiera fueron investigados qué decir perseguidos qué decir castigados qué decir penados

por eso traemos también para contrarrestar esa visión de los tribunales por eso traemos también la opinión de órganos internacionales

por parte del señor maneiro personas de autoridad que hablaban de fascismo y de neofascismo aipatzen zenuen

por el derecho de conquista no es extraño que usted defienda hoy esta posición hemen

el partido nacionalista vasco cree que con el ordenamiento jurídico actual y

se da cabida a las peticiones de los querellantes eso sí si los poderes públicos del estado respetaran lo que recoge en su propio ordenamiento jurídico

establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por españa

que son crímenes de la humanidad que estos crímenes son imprescriptibles y que además

por todo eso el partido nacionalista vasco apoya esta querella por todos esos principios y por todas esas

reconocidas dentro del ordenamiento jurídico que no están aplicando los poderes del estado no solo el gobierno tampoco los jueces y los magistrados

verdad justicia y reparación también son principios recogidos en convenciones europeas firmadas

verdad justicia y reparación que no deben de haber sido satisfechos cuando una y otra vez se dirigen a diferentes tribunales a hacer el peregrinaje para ver reconocidos estos derechos por lo tanto creemos que el partido popular en vez de quedarse con términos y palabra sueltas debería leer la proposición no de ley en toda su totalidad

la ausencia de investigación de los crímenes de la guerra civil y del franquismo constituyen incumplimiento por parte del estado en su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación en los casos de crímenes de derecho internacional mila esker

gracias señora presidenta señora vaquero no hay ausencia de investigación

investigación la prevé y la contempla las propias leyes que tenemos la ley de memoria histórica que se aprobó hace cuatro años es decir que por ahí hay una investigación histórica una investigación científica en relación

eso forma parte de la verdad mire señora vaquero nuestra posición ha quedado clara en la intervención y en nuestra enmienda

a cuál era el espíritu de la transición me he referido

a la normativa a las normas a nuestra constitución a la ley de amnistía a las demás leyes

estoy de acuerdo con el señor arzallus en su intervención del catorce de octubre de mil novecientos setenta y siete se lo tengo que volver a repetir porque estoy perfectamente de acuerdo él definió en

esencial para nuestro futuro y efectivamente a partir de ahí se ha construido por mucho que a muchos les guste volver a distorsionarlo

hablar de temas que no nos llevan a ninguna parte que hay que mirar al futuro

la verdad es que es impresionante oír al portavoz de bildu

lo vómitos de demagogia en los que son capaces de entrar como siempre

el señor arzuaga el portavoz de bildu

hablando de respeto a las reglas del juego

hablando del respeto a las reglas del juego el señor denunciando el régimen militar el régimen dictatorial

pero si señor arzuaga si usted es uno de los últimos vestigios del franquismo

eta es uno de los últimos vestigios del franquismo ustedes son el símbolo del fascismo hoy en españa ustedes

ustedes y su negativa a reconocer los crímenes de eta

haya sufrido en este país lamentablemente es así así que

en las claves de las leyes ustedes son eso

fascismo el último vestigio del franquismo eso son ustedes

aprovechan este momento en relación con un tema son contradictorios el partido socialista

el otro día en sestao se abstuvo en relación con esta misma pretensión así que en ese sentido yo creo que lo que tienen que hacer es

en debates parlamentarios recientes en el congreso de los diputados en relación con estas cuestiones que han sido claros inequívocos y sobre todo a la hora de votar en contra

que es lo que podría dar salida jurídica a alguna de las pretensiones que reclama en texto de la proposición no de ley así que hay una profunda contradicción yo quería

aquel histórico debate y posición

en el catorce de octubre de mil novecientos setenta y siete y me gustaría decir lo que decía marcelino camacho

de españa cómo podríamos reconciliarnos berbotsa efectivamente miembro del partido comunista

reconciliarnos los que nos estábamos matando los unos a los otros si no borramos ese pasado de una vez para siempre

precisamente los comunistas que tantas heridas tenemos que tanto hemos sufrido hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en la vía

esto forma parte de su historia también o sea que es así es que claro es que luego

hay que venir cíclicamente con el tema del franquismo pues hay que tratar de buscar cuñas

en relación con este tema de la investigación de las querellas yo ya he justificado la posición en relación con nuestro ordenamiento jurídico pero

decía en una reciente intervención en el dos mil once en relación con la reforma y la modificación de la ley de amnistía precisamente para estas cuestiones decía el señor

no vamos a engañar a la opinión pública a quién vamos a juzgar exactamente hay sujetos personas concretas que puedan ser llevadas a los tribunales por esos delitos

y concluía con que no podía hacerse y se abstenía en relación con esta cuestión así que en definitiva

y así es la cuestión muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eta amaitzeko mistoa upyd taldearen

sí señora presidenta señora presidenta quiero decirle que aquí se han dicho cosas muy graves el portavoz

ha dicho que upyd apoya y cobija a criminales el portavoz de eh bildu es decir quien apoya y cobija a criminales

hace unos minutos que upyd y el partido popular apoya y cobija a criminales cosa que es absolutamente inadmisible menos viniendo de un portavoz de un grupo que sí apoya y cobija a criminales a los criminales

nos parece una nueva barbaridad que se ha cometido

ha permitido los fascistas de eh bildu

han acusado a dos partidos políticos democráticos de apoyar y cobijar a criminales precisamente los que apoyan y cobijan a criminales y nosotros no podemos

nosotros apoyamos la transición democrática nosotros apoyamos la ley de amnistía apoyamos la constitución española y apoyamos la ley de memoria histórica todo esto es lo que nosotros apoyamos todo aquello que nos permitió abrir un periodo democrático sin precedentes como he dicho al principio solo enturbiado por el terrorismo de eta y sus servicios auxiliares

el último reducto efectivamente del franquismo nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna amaitu da eztabaida

presidenta lehendakari señorías buenos días a todos traemos hoy los socialistas una proposición de ley de vivienda

por las cual traemos esto para que sea tomada en consideración y las razones por las cuales vamos a recabar y pedir su apoyo a dicha proposición en primer lugar queremos destacar que esta es no la única pero una de las pocas comunidades autónomas que no tiene a día de hoy ley de vivienda pese a que su estatuto de autonomía el artículo diez barra treinta y uno habla de que es una competencia exclusiva y pese a ello

en la comunidad autónoma que la hay profusa y dispersa y solo ello por sí mismo ya sería suficiente razón para llevar a cabo

que aglutinara toda esa normativa sin embargo lo que hoy en día

es la situación que estamos viendo día a día por la cual muchos ciudadanos están viendo cómo pierden sus viviendas como consecuencia de la crisis

de leyes hipotecarias muchas de las veces abusivas como ha establecido la unión europea y en esta coyuntura la constitución española

especial importancia así lo destacamos en nuestra exposición de motivos en la que también citamos la declaración universal de los derechos humanos

del dos mil y es que vivimos tiempos en los que los ciudadanos pierden este derecho a la vivienda y son lanzados a la calle sin muchas contemplaciones porque a pesar de que la constitución otorga este derecho

como un bien de consumo o como un bien de especulación pero es que además siguiendo con la constitución española en su artículo treinta y tres plantea la función social de la propiedad y el artículo ciento veintiocho establece que la riqueza del país está subordinada al interés general

es en los que se inspira nuestra proposición de ley que hoy traemos aquí hay además una resolución del parlamento muy reciente del once de junio sobre vivienda

hay un montón de considerandos y un montón de proposiciones pero su primer considerando ya nos dice

y es requisito indispensable para una vivienda digna

digna y adecuada constituye una obligación internacional de los estados miembros podríamos leer todos los considerandos y todas las proposiciones eso agotaría nuestro tiempo de argumentación pero basta decir finalmente que establece en sus proposiciones

a que garanticen de verdad el derecho de acceso a la vivienda por lo tanto y de forma sucinta la proposición que traemos

qué es un derecho subjetivo aquel por el cual realmente el ciudadano poseedor de tal derecho puede instar puede reclamar bien ante la administración bien ante la jurisdicción el ejercicio de tal derecho y nosotros planteamos que este derecho se establezca en base a la ocupación legal y estable de vivienda digna y adecuada por aquellos colectivos

la segunda gran cuestión es la función social de la vivienda como decíamos constitucionalmente se reconoce el hecho de que la riqueza

y precisamente por esta razón definimos lo que es la función social mediante la técnica legislativa de exclusión diciendo cuándo no se cumple esta función social así por ejemplo el incumplimiento de deberes de conservación y mantenimiento en lo destino de la vivienda

al uso residencial manifiesta desproporción entre las condiciones exigibles de acceso a la vivienda protegida y la capacidad económica sobrevenida uso inadecuado de la vivienda incumplimiento del deber de conservación y se define también lo que es vivienda desabitada que es justamente una de las situaciones que exige mayor reproche social y que incumple la función social de forma más flagrante el ejercicio de este derecho de adquisición

se recogen las actuaciones a seguir en la ley para garantizar el efectivo cumplimiento de la función social de la vivienda que serían el ejercicio del derecho de adquisición preferente y del desahucio administrativo expropiación por incumplimiento de la función social venta sustitución forzosa órdenes de ejecución

en definitiva y desde una visión política lo que no es admisible es que en esta situación el ocho coma cuatro por ciento del parque de viviendas de la comunidad autónoma es decir ochenta y cuatro mil viviendas permanezcan vacías

posiblemente ahora haya un número mayor en la situación en la que estamos esto no es tolerable para los socialistas desde luego ni admisible y requiere una intervención de los poderes públicos para poder atajar esta situación esta sería de forma resumida nuestras razones para traer hoy aquí

tenemos que tratar de contestar al criterio desfavorable que ha mantenido el gobierno respecto de nuestra proposición de ley por lo tanto las razones que vamos a exponer tienen que ver también en forma de contestación a lo que ha sido el criterio desfavorable del gobierno

se refiere a la necesidad de partir de un gran consenso social y sobre todo a la necesaria participación de eudel

con toda franqueza que es una excusa de mal pagador porque como reconoce

el consejo de gobierno donde establece ese criterio desfavorable

y ese proyecto de ley que es la base troncal de toda esta proposición sí que contó con consenso social contó con tal consenso social que incluso

logró nada más y nada menos que todo un reconocimiento y un premio de naciones unidas al servicio público que es el reconocimiento más prestigioso a la excelencia en el servicio público también hay que decir que eudel dio

fue un poco también la razón por la cual se dilató el tiempo de

en sede de gobierno porque eudel no sabía o no contestaba finalmente dio su opinión lo cual quiere decir que eudel a estas horas ya tiene opinión formada

el segundo argumento en contra está relacionado con el echo de que el proyecto de ley

va a influir en todo esto pues no creemos que vaya a influir porque

que ya se ha tenido en cuenta también en su confección a la hora de preparar esta proposición de ley y por lo tanto no va a haber mucha incompatibilidad y además ese proyecto de ley tiene un objeto que es mejorar

es asegurar el derecho garantizar el derecho de acceso a la vivienda es decir dos objetos que pueden complementarse pero que son distintos

el tercer argumento referido a los condicionamientos económicos y presupuestarios esto es una tapa que vale para todos los pucheros

y por lo tanto ya llevamos unos cuantos años la legislatura anterior estuvo en todos su recorrido marcada por la crisis y no fue óbice para que el gobierno no planteara en este caso un proyecto de ley

estrecheces económicas y presupuestarias por otra parte los derechos existen o no existen en función de los presupuestos nos parece que no los derechos existen por encima de todo y el último argumento al que no me va a dar tiempo

pero como no me va a dar tiempo voy a detenerme en

porque creo que merece la pena un análisis un poco más detallado hay que decir en todo caso

los argumentos que ha manejado el gobierno en sus criterios desfavorables no nos parecen en ningún caso de recibo y lo que plantean es

es lo que llamaríamos la parálisis por el análisis lo que creemos es que hay que intervenir

votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley traída a esta cámara

socialista y no lo haremos ni para castigar a este gobierno ni para cosa parecida pensamos que es buena idea

hacer la mejor ley de vivienda posible y pensamos que esta proposición puede ser una buena base para que todos los grupos vía enmiendas logremos

la razón fundamental es que euskadi no tiene una ley de vivienda y que euskadi necesita una ley de vivienda y que este texto que nos trae el grupo socialista sin ser perfecto puede ser la base de una futura buena ley de vivienda que aprobemos en los próximos meses en este parlamento ya digo con las aportaciones vía enmiendas de todos los grupos parlamentarios lo cierto es que durante demasiado tiempo los distintos gobiernos han sido incapaces de traer a esta cámara un proyecto de ley de vivienda

que solucionara los problemas relacionados con este asunto que sufren

durante toda la pasada legislatura el gobierno socialista estuvo trabajando en un proyecto de ley que finalmente presentó en junio de dos mil doce y que decayó con la disolución del parlamento obviamente aquel proyecto de ley podría haberse presentado antes pero también hay que reconocer que el gobierno

trabajó mucho en aquel proyecto se hicieron multitud de reuniones participaron asociaciones promotores consumidores instituciones ayuntamientos se debatió mucho y se llegó a ciertos acuerdos no compartidos por todos pero que en todos caso nosotros valoramos la

es semejante al proyecto enviado hace un año por el gobierno

esta proposición de ley es un paso en la buena dirección pensamos que es un

se reconoce en ella el derecho subjetivo a la ocupación legal estable de una vivienda a favor de aquellos que carecen de los recursos económicos precisos para acceder a una vivienda se atribuye a los titulares la posibilidad de recurrir a los tribunales para hacer efectivo

subjetivo se incluye asegurar el derecho a la vivienda a las personas afectadas por desahucios procedentes de ejecuciones hipotecarias para que puedan seguir ocupando su vivienda

de la misma que obviamente podría corregirse así pensamos hacerlo nosotros vía enmiendas se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimiento de desahucio el proyecto

por una prestación económica es decir que el beneficiario pueda tener una ayuda económica para acceder a un arrendamiento fuera del mercado protegido es una

en la promoción pública en ella no solo se asume el derecho a una vivienda digna sino también a un entorno urbano o rural digno y adecuado donde se ubiquen

importancia la rehabilitación de edificios la regeneración de espacios urbanos y la revitalización económica y social de zonas ya

y se regula la vivienda deshabitada y se regula el régimen jurídico de las viviendas de protección social las viviendas tasadas y los alojamientos dotacionales en fin pensamos como digo que es un buen paso en la dirección una propuesta legislativa sobre uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos por eso es importante que también el país vasco tenga cuanto antes

y muy mejorable puede ser la base pensamos que puede ser la base

la mejor ley de vivienda posible y de ahí nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley creemos que es conveniente comenzar ya el debate de esta ley llevamos demasiado tiempo perdido los grupos parlamentarios si finalmente se toma en consideración que intuyo que sí

de plantear cuantas enmiendas consideremos oportunas y modificarla en función de las mayorías que se conformen nosotros por lo tanto somos partidarios de empezar ya el trabajo ya digo esta proposición que es claramente mejorable y que nosotros

vía enmiendas podrá ser mejorada también por todos los grupos parlamentarios no compartimos tampoco nosotros los argumentos del gobierno para mostrar su criterio

ciertamente flojos ni la promesa de que el gobierno presentará su proyecto en breve

ni los condicionamientos económicos que se señalan que hayan cambiado ni que esté en fase de elaboración pues la ley de rehabilitación regeneración y renovación

argumentos de peso para mostrar el gobierno su criterio desfavorable en fin por todo esto nosotros somos partidarios de decir que sí y

en consideración de este proyecto ya digo para que pueda ser la base de la mejor ley de vivienda posible a partir de ahora nos toca lógicamente trabajar a los grupos

podamos mejorarla creo que esto es lo que reclaman los ciudadanos y de ahí ya digo nuestro voto favorable nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos bien algunas de las manifestaciones que se han hecho aquí este grupo no puede por menos que compartirlas porque ya las hemos reiterado en esta cámara en otras ocasiones siempre hemos insistido en la necesidad de

legales precisos que permitan hacer efectivo el derecho a contar con una vivienda digna y adecuada ese derecho reconocido en el artículo cuarenta y siete de la constitución española

de la comunidad autónoma de euskadi tal y como recoge el número treinta y uno del artículo diez de nuestro estatuto y en este sentido como decía

con lo que dice la proposición que se presenta que los poderes públicos deben implicarse son los poderes públicos los que deben ser encargados de dar contenido a ese derecho las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y articulando un sistema legal que lo haga posible y los datos de necesidad de vivienda siguen estando ahí

además la demanda de vivienda en alquiler va en aumento constituyendo actualmente un cuarenta y cuatro por ciento de la demanda y hay que tener en cuenta también que la resolución del problema de la vivienda se ha producido en casi la mitad de los casos concretamente en el cuarenta y ocho coma cinco por ciento se ha solucionado como decía a través de una vivienda adquirida en el mercado libre y ello a pesar de que los inscritos en etxebide el setenta y siete por ciento señala que no está en disposición de adquirir

por ello como décimos los poderes públicos deben actuar para dar solución

asequible y en nuestra comunidad esta acción no se ha dado no contamos con los instrumentos suficientes y adecuados para que todos los vascos puedan acceder a viviendas asequibles

por ello nosotros queremos decir en primer término y que esto quede claro que nosotros consideramos necesario que se traiga cuanto antes una ley de vivienda y en este sentido

que el grupo socialista presentó el pasado mes de abril en la que se pedía precisamente

en todos los debates que se han producido en esta cámara en la última legislatura hemos mantenido esa necesidad

porque materializar el derecho a la vivienda está indisolublemente unido a la regulación del planeamiento estimamos que los dos instrumentos

debe abordarse su estudio de forma conjunta porque una buena política de vivienda pasa necesariamente por una buena política del suelo

mala ley es una ley que es necesario modificar y por eso cuando ustedes señores socialistas trajeron a esta cámara una proposición de ley de modificación de esa ley en la anterior legislatura nosotros la tomamos en consideración dimos nuestro voto a favor de esa toma en consideración pero parece que ese interés

y mientras que sí han presentado la proposición para que se traiga de una ley de vivienda sin embargo la de la modificación de la ley del suelo

insistimos en que esta ley de vivienda parece ser una meta a la que nunca acabamos de llegar su presentación es una promesa incumplida por parte de todos

porque esa presentación a la que ustedes seguro que aludirán el señor

señor aldaiturriaga lo hará fue una presentación meramente técnica

en algo que se empieza ya a convertir en una costumbre en esta cámara es cierto que la octava legislatura el gobierno nacionalista nos presentó un proyecto pero lo presentó pocos días antes

y en esta cámara como usted ha dicho señor itxaso se presentó

pero la fecha de presentación fue el dieciocho de junio del año pasado y eso después de prometerse que se iba a presentar esa ley

todas estas ofertas eso sí acompañadas de la respectiva foto esta parlamentaria señorías interpeló el año pasado al consejero de vivienda para preguntarle por la fecha de presentación de esta

iniciativa a esta cámara había sido porque había constituido un verdadero vía crucis la elaboración del proyecto finalmente después de pasar todas las estaciones de ese larguísimo vía crucis

de dos mil doce no pudiéndose tramitar porque en agosto fueron convocadas las elecciones por tanto

tres años en presentar un proyecto de ley de vivienda y cuando la presentaron sabían que era mucho más que probable que no iba a ver la luz ahora eso sí ahora le han entrado las prisas

primero como le he dicho presentar una proposición no de ley solicitando al

y nosotros presentamos una enmienda diciendo que por supuesto era necesario que trajese la ley

el contenido lo daría quien le corresponde el impulso que es el gobierno y nosotros después vía enmienda corregiríamos lo que estimásemos que no era conveniente ahora usted

por el que tuvieron que pasar los socialistas y esta proposición es no muy parecida es un calco

que presentaron salvo en dos aspectos en el artículo setenta y tres y en la disposición adicional séptima relativas a la expropiación de uso en el caso de las ejecuciones hipotecarias ese apartado no aparecía en el proyecto

los desahucios empiezan el año pasado este año perdón en el año dos mil trece que el año pasado

evidentemente no es así y la razón pudiera ser

son mucho más imaginativos que los socialistas al frente del gobierno vasco y aquí esa solución en euskadi

la solución dada por el gobierno andaluz pero en el resto como les decía la proposición es un calco del fallido proyecto de vivienda que reitera

del anteproyecto que se presentó en enero de dos mil once anteproyecto que no se gestó bien y fruto de ese trabajo previo de negociación su presentación no concitó

y también por parte del grupo nacionalista vasco y el consenso señor itxaso no es una excusa el consenso en un tema tan importante como este nosotros consideramos que es una

el consenso le importaba poco en ese momento ya contaba con que probablemente ni el partido nacionalista vasco ni el partido socialista iban a aprobar aquel proyecto pero no le importó

no con la intención de aprobarse porque poco le importaba como digo

por acordar con los grupos políticos sino para cubrir el expediente y para que ustedes hoy puedan

presentó un proyecto de ley de vivienda ahora que el arco parlamentario ha cambiado

con los de que parecen ser sus socios naturales se trae a esta cámara en forma de proposición no de ley a principios de la legislatura pasada aralar presentó también

nuestro grupo en esa ocasión votó en contra de la toma en consideración y dando unos argumentos que ustedes compartían y era que un instrumento de estas características un instrumento tan importante debía o debe regirse los principios que regulan las disposiciones de carácter general que debían ir acompañados de todos los informes preceptivos y que debía ser fruto de un acuerdo amplio y como digo que le acompañasen los correspondientes informes y dictámenes de su encaje económico y jurídico y además dimos un voto de confianza al gobierno socialista de entonces para que fuese él el que presentase

a estas alturas no sabemos si la decisión fue acertada

no se cumplieron la legislatura acabó sin proyecto y nos encontramos sin ley de vivienda y este grupo

como esto es un calco de la iniciativa anterior

están ahí y están en si uno va a la hemeroteca de este parlamento

puede conseguirlo más allá de la necesidad de esta

tiene muchas muchas carencias si finalmente es tomado en consideración será objeto de numerosas enmiendas

porque este proyecto constituye una prueba palmaria del fracaso de la política de vivienda no es suficiente con tener competencias con reclamarlas a todas horas es necesario gestionarlas y es necesario utilizar esas competencias para dar soluciones a los ciudadanos y en materia de vivienda un gobierno y otro

una gestión cuya eficacia ha brillado por su ausencia

lo que hace es esconder el fracaso absoluto de la política de vivienda del gobierno socialista en el proyecto se pone de manifiesto de forma y usted lo ha dicho aquí de forma muy rimbombante que a partir de ahora el derecho a la vivienda va a ser un derecho subjetivo que puede ser exigido jurisdiccionalmente

sino en la satisfacción porque el derecho a la vivienda se lo he dicho está reconocido constitucionalmente la cuestión es que los poderes públicos actúen para que ese derecho pueda ser efectivo y porqué no ha sido efectivo hasta ahora señor itxaso qué sucede que es necesario que se tenga que exigir a los tribunales ahora cuando se pude exigir a los tribunales es cuando se va a satisfacer ese derecho y antes no y además he de decirle una cosa ese derecho que se establece no es un derecho universal

y solo determinadas personas van a poder acceder y van a poder exigir jurisdiccionalmente el cumplimiento de ese derecho hay otras personas que quedan fuera y otras personas a las que se les va a seguir complementando su necesidad de vivienda a través de la compensación complementaria de vivienda y eso a pesar de que en la ley que regula la prestación complementaria de viviendas se decía que esta estaría en vigor

una normativa de vivienda esta proposición además ante la imposibilidad de responder

y ante lo que pone de manifiesto en al propia iniciativa de la insuficiencia del parque de viviendas de protección pública a corto plazo

justificaré lo que hace es haciendo gala de una política absolutamente intervencionista trasladar la carga al ámbito privado existe de viviendas de protección oficial desocupadas en este momento pero eso sí se penaliza a los dueños privados de inmuebles por no venderlos por no ponerlos en el mercado se les obliga a ponerlos en alquiler

que es mejor incentivar que penalizar que es mejor llevar a cabo medidas de índole positivo que lleven a los propietarios de esos inmuebles a ponerlos en el mercado

pero no sabemos como le digo si casi ese millar de viviendas de protección oficial vacías en este momento tendrán que pagar también ese canon de vivienda desocupada

el plagio de la normativa de la andaluza de expropiación de uso temporal

pero cuánto va a costar a la administración vasca estas expropiaciones porque eso ustedes no lo dicen porque la posibilidad de evitar que estas personas tengan que abandonar sus domicilios tras un lanzamiento está recogida en la regulación que ha hecho el gobierno del partido popular

también se establece una nueva distribución de las acciones a realizar entre las distintas instituciones del país vasco entre ayuntamientos y diputaciones forales

llegó tan tarde que alguno de los informes que acompañaban al proyecto lo que dicen

no existe no voy a entrar más en el contenido señor itxaso porque si esta

es tomada en consideración será objeto de un debate posterior pero sí le diré

va a ofrecer muchas pegas por todo lo dicho anteriormente este grupo no puede mostrar su apoyo a la toma en consideración de esta proposición eskerrik asko

mahaiburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok eguerdi on la iniciativa que hoy nos presenta el grupo socialista la proposición de ley de vivienda

con otra iniciativa presentada por el mismo grupo en la cámara el pasado veintitrés de abril sobre medidas a adoptar para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda

un proyecto de ley de vivienda que tenga por objeto garantizar el derecho al disfrute de una vivienda digna no obstante sin esperar al resultado de esta iniciativa

el grupo socialista presenta veinte días después una proposición de ley sobre vivienda eso sí

de ley es el mismo que el anteproyecto de ley aprobado por el gobierno

con la tradición disolvente de los proyectos de ley sobre vivienda y urbanismo en nuestra comunidad

una vez celebradas las elecciones autonómicas la composición de esta cámara ha variado

comportamiento del grupo socialista de presentar esta iniciativa nos parece cuando menos osado y en cualquier caso contrario a la cortesía parlamentaria una vez que el gobierno ha manifestado que va a proceder a la elaboración del proyecto de ley analizar

nos lleva a hablar del procedimiento de elaboración de las disposiciones generales

que hoy tramitamos que hoy se propone tramitar se refiere no a una materia cualquiera sino que lo hace sobre una problemática de enorme actualidad e importancia social como es la relativa a la vivienda en nuestra comunidad autónoma

entendemos que esta no es la forma más adecuada de abordar la citada problemática convendremos todos que el objetivo principal

capaz de resolver los problemas que en relación a la vivienda se plantean en nuestra sociedad el ejercicio de una actividad de esta naturaleza exige que la misma la proposición de ley que hoy analizamos vaya dirigida a dar respuesta a esta demanda en una sociedad compleja

al respecto y en primer lugar ha de tenerse en cuenta la diferencia temporal existente entre el momento en que el anterior ejecutivo tomó la decisión de elaborar el proyecto de ley que ahora se nos presenta como proposición de ley y el transcurrido hasta la fecha

adoptó la decisión de iniciar el proyecto en el año dos mil diez y nos hallamos a mediados del dos mil trece

que aconsejan nos replanteemos aquellos criterios con los que se encargó la elaboración del proyecto de ley el momento

la base de la proposición de ley que nos realiza el grupo socialista es como si nada hubiese ocurrido un modelo de producción de vivienda de protección pública

en un segmento de nuestra sociedad los criterios productivistas de construcción de vivienda de vpo que siguen manteniéndose en la proposición de ley nos han llevado por ejemplo a que dispongamos de viviendas de vpo de promoción pública edificadas en los municipios donde no existe una necesidad de vivienda contrastada en segundo lugar en una epa como la presente se exige que actuemos con sometimiento al filtro económico que nos impone la actual situación de crisis en esta proposición del grupo socialista se incluye

con un impacto económico enorme en las haciendas de las administraciones afectadas principalmente el gobierno y los ayuntamientos el anterior gobierno fijaba el impacto presupuestario asociado al derecho subjetivo de la vivienda

de euros basados en una información que la propia oficina de control económico del gobierno consideraba

un mayor endeudamiento o una alteración de las prioridades del gasto público del gobierno manifiesta también

pero además de la exigencia a esta proposición de ley de un mínimo principio de eficiencia

de más reciente elaboración pero no menos importante por ello como es el de la participación en este sentido

de las organizaciones y asociaciones a los que se debe dar audiencia para alcanzar una conciliación previa no solo técnica sino fundamentalmente de orden político

una importantísima carencia no sabemos la opinión el parecer que les merecen a nuestros municipios el contenido de esta iniciativa téngase en cuenta que en el documento presentado por el gobierno el grupo socialista ahora impone importantísimas obligaciones como digo a nuestros municipios

lo cierto es que no conocemos su opinión y no se trata ni de cumplir mecánicamente el procedimiento

por eso nuestro grupo propone alcanzar un acuerdo interinstitucional por la vivienda con el objeto de promover la cooperación y colaboración en esta materia

u otros colectivos que trabajan por la materialización de una vivienda digna hemos de ser capaces

por eso entendemos que se requiere un consenso político previo entre todos los agentes sociales e institucionales que interviene en la configuración del derecho a la vivienda es conveniente que entre las principales fuerzas políticas del parlamento seamos capaces de formalizar un pacto en esta materia

y desde luego la presentación de esta iniciativa no es la mejor manera para alcanzar ese objetivo señor itxaso por eso también es preciso recordar que los partidos no tenemos la exclusiva en esta materia una materia en que está en juego la convivencia y el modelo social porque no se trata solo de un derecho constitucional sino que además afecta a las condiciones de vida de nuestros conciudadanos

también otros defectos el siguiente y también muy importante es que nos hallamos ante un documento que prevé ser normativo y que se refiere a la vivienda protegida

lamentablemente no define lo que se entiende por vivienda protegida no se establecen cuáles son los beneficios económicos sobre las limitaciones del derecho de propiedad de estos bienes no se realizan el menor esfuerzo por decidir las condiciones legalmente exigibles

una respuesta a esta pregunta en su turno de réplica tampoco se dice nada

sobre el patrimonio es decir cuando se traban bienes o derecho del apremiado para satisfacer un crédito de derecho público

estos bienes se hallan las viviendas de vpo o el reintegro de la financiación en caso de venta

todo esto que entendemos es básico en una ley sobre vivienda protegida sin embargo en el texto presentado

ante una propuesta política que no es de recibo señor itxaso se supone

que en su disposición final séptima nos dice que serán viviendas de protección pública las que se definan en la ley del suelo señor itxaso ley en la que a su vez

es el que defina la ley de vivienda que como ya hemos dicho

un peloteo inadmisible señor itxaso otro aspecto de esta proposición es que la estrategia de vivienda en la que seguramente todos coincidimos no va más allá que los enunciados teóricos

la concepción de una vivienda como un bien de inversión más que como bien de uso eso es cierto

el alquiler como herramienta adecuada para potenciar ese valor de uso de la vivienda

asimismo falta no se ha diseñado una estrategia de fomento para evitar la existencia de viviendas desocupadas

hacía referencia más allá del canon de

llama también la atención que no contenga ni proponga ni una sola medida de carácter fiscal esta proposición de ley se apoya en una falacia contenida a la ley del suelo del dos mil seis que

y es la relativa a que el precio del suelo condiciona el precio de la vivienda cuando en realidad es

y la prueba lo tenemos en lo que ha ocurrido estos años el descenso de los tipos de interés provoca un aumento de la demanda de la vivienda

suben los precios una subida de precios de vivienda hace que suba el precio del suelo y una subida al coste del suelo provoca una subida del precio de la vivienda

hay que ir a otro modelos señorías hasta ahora el modelo ha sido ayudar al sector privado a cambio de una limitación administrativa de los precios

por otras de carácter no permanente revisables y directas a las personas que pretenden acceder a una vivienda finalmente decir también que hay otros argumentos que aconsejan la no tramitación de esta iniciativa en los actuales momentos nos estamos refiriendo a la tramitación en el congreso de los diputados del proyecto de ley rehabilitación regeneración y renovación urbana que contrariamente

esperar a la regulación estatal para elaborar una normativa propia es aconsejable en las circunstancias actuales esperar a la aprobación de ese proyecto analizar el tratamiento de los aspectos básicos de la legislación estatal

no elaborar ahora una ley para tener que modificarla pasado mañana

se opone a la tramitación de esta proposición de ley del grupo socialista

nosotros no estamos como gobierno para echar por la borda trabajos anteriores somos receptivos al trabajo realizado en las legislaturas anteriores

de este mismo año donde dije digo dije diego señor maneiro agradezco el apoyo a la toma en consideración

no puedo hablar en tres minutos treinta o lo que quede ahora de todas las cuestiones que se han planteado

esta proposición de ley no estamos hablando de los contenidos y eso nos llevaría muchísimo más tiempo y eso tendrá lugar en su momento oportuno y efectivamente una ley se sabe como entra pero no se sabe como sale del debate parlamentario surgirá la ley que mejor

en ese sentido señora beitialarrangoitia los socialistas estamos comprometidos

a llevar adelante los trabajos necesarios para que esa ley itxaso jauna

maneiro jaunak no va intervenir te regala los minutos por tanto tienes más tiempo tres minutos y medio muchas gracias por su gentileza señor maneiro eso me permitirá

otra cuestión que no estaba prevista inicialmente como digo ese es nuestro compromiso el llevar a cabo en el trámite de debate y en el trámite de discusión de las diferentes enmiendas el compromiso por sacar una ley

efectivamente el texto que nosotros presentamos es un texto que está trabajado

que ha ido acompañado cuando entonces era un trabajo que planteaba el gobierno

pero hoy es una proposición de ley señor aldaiturriaga es decir no vamos a confundir los trámites que se siguen para un proyecto de ley para una proposición de ley eso

y no se nos puede pedir a los grupos que nos inhibamos de la iniciativa que nos corresponde y mucho menos que llevemos a cabo una actividad pasiva o de desidia ante lo que es

la necesidad de impulso al gobierno impulso al gobierno que tan pronto dice una cosa como dice la otra porque vamos a ver en el debate del calendario legislativo ni se mencionó para nada que estaba entre las prioridades la cuestión de una ley de vivienda y ahora resulta que en la contestación nos dice que están trabajando en un anteproyecto pero bueno es que en fin por no traer a colación el hecho de que en el mismo consejo de gobierno

resulta que se da un criterio favorable al día siguiente entonces vemos que el gobierno está presentando síntomas alarmantes y preocupantes

señora llanos no puedo responderle en el tiempo que me queda aunque se haya ampliado a todas las cuestiones que usted ha planteado pero es que además sería innecesario porque es que realmente después de decir que es necesario dotarnos de un instrumento dice que no lo toma en consideración pues bueno

tenemos las espaldas anchas y sabemos que tenemos que cargar con muchas de esas cosas pero lo cierto es que hoy aquí venimos con unos deberes hechos con una proposición de ley que por supuesto que es perceptible como casi todas las cosas en esta vida naturalmente que sí

tendrá que ser fruto lógicamente de los consensos suficientes para que puedan salir en los términos adecuados cosa que a día de hoy está por ver porque eso es fruto efectivamente de los debates que vendrán después por lo tanto

como digo nuestro compromiso es el de trabajar en el estudio en profundizar aquellas cuestiones entendemos que el texto está elaborado y está trabajado con suficiencia porque se le ha dedicado mucho tiempo pero obviamente es un trabajo de una parte y lógicamente

digamos ponderarse mucho más con los planteamientos que los demás grupos

ese compromiso por mucho que nosotros lo hagamos no tiene garantías las garantías serán las que surjan de las mayorías en cada momento voten las diferentes enmiendas pero si lo que quiere es saber realmente con qué espíritu acometemos nosotros este proceso

con fuerte contenido social que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos que dé respuesta por otra parte a los mandatos de las instituciones aguas arriba que nos están diciendo que esto es lo que hay que hacer y lo que nos dice el gobierno y nos dice el grupo parlamentario que lo apoya

es todo muy necesario pero vamos a dejarlo para más adelante si el gobierno tiene

adquirir forma de enmiendas para que sus contenidos su espíritu lo que le anima en forma de enmiendas si alcanza los consensos necesarios

y decía en la primera intervención que me iba a detener la verdad es que no quiero ser reiterativo pero el gobierno

criterios que ha mostrado desfavorables a esta proposición de ley no ha podido tener

por las cosas que he explicado antes y finalmente por el último argumento que como digo

porque tan pronto dice una cosa como dice otra señora llanos el informe de eudel

que impidió aunque luego cargue con las culpas el partido socialista de que no hace las cosas a tiempo pero precisamente por tener la atención de esperar a que estas ocho hojas llegaran después de unos meses hay un informe hay un informe que da una opinión

al verdadero objeto de la ley que es la función social el derecho subjetivo y todas esas cosas habla de otras cosas pero efectivamente

nada más y gracias a los grupos que van a tomar en consideración nuestra proposición eskerrik asko itxaso jauna

gracias señora presidenta de nuevo por empezar

con relación a la modificación de la ley del suelo aquí se establece como

esa regulación sacrosanta de que determinados estándares se tienen que cumplir pero es que los estándares que estaban establecidos han servido para solucionar el problema de vivienda y como decía no solo el problema de la vivienda protegida que evidentemente tiene que haber

a un precio asequible porque lo que es cierto es que hay ciudadanos que por poco no pueden entrar en el mercado de vivienda protegida pero sin embargo vemos que en este momento los precios de la vivienda libre siguen siendo elevados

realmente han servido yo creo que no con lo cual hay que hacer una revisión porque además como he dicho en alguna otra ocasión además encorsetaba esa ley encorsetaba a los ayuntamientos los ponía a todos por igual daba lo mismo que fuera un municipio pequeño que un municipio grande daba igual las necesidades de vivienda que tenía o que no tenía todos tenían el mismo tratamiento y creo

debe de ser contemplada en la futura ley del suelo en la reforma que esperamos que llegue mire señor itxaso la verdad es que

choca habla usted de coherencia pero vamos a ver si es que usted por coherencia no tendría que haber presentado esta proposición por coherencia ustedes no tendrían que haber

sí pero esta no porque se lo he dicho en mi primera intervención aquí se trajo la proposición de ley de aralar de vivienda y ustedes

dos motivaciones para votar en contra de esa toma en consideración dos una el procedimiento que ustedes defendieron que debería de ser el procedimiento establecido para las disposiciones de carácter general con los informes y trámites y dos el contenido

no lo hubieran traído aquí porque se saltan el procedimiento que ustedes exigían

eventuales socios con los que creen que pueden sacar esa proposición pero ustedes saben que ese contenido no tenía el consenso y por eso tardaron ustedes tanto eso que le achacan ahora a los señores nacionalistas y al gobierno

eso que parece ser como yo decía una costumbre en esta cámara que no se cumple en esta ocasión ustedes lo cumplieron

antes de finalizar junio de dos mil diez íbamos a ver aquí la ley de vivienda y no la trajeron y la que trajeron

simplemente para poder ahora colgarse la medalla para hacerse la foto en ese momento y ahora colgarse la medalla de que la han presentado sabían que no iba a resultar aprobada porque ni el grupo nacionalista vasco ni el grupo socialista en ese momento la iba a apoyar y además lo sabían porque se lo habíamos dicho

porque él mismo dijo que no le importaba que no le importaba tener el consenso y ya le digo el consenso no es una excusa en este tema es algo muy importante

porque si ustedes hubieran traído ese proyecto de ley como le digo hubiéramos presentado una enmienda a la totalidad

una vez que se inicie el trámite parlamentario solo podemos presentar enmiendas parciales

muy muy mejorable porque está lleno de eso que tanto les gusta a ustedes

los anuncios las fotos y las afirmaciones demagógicas como le digo la función social de la vivienda y el derecho subjetivo esas dos afirmaciones rotundas pero que si uno va a la legislación concreta no se sabe si se van a conseguir porque tienen muchos reparos reparos que no solo pone

repasando la documentación que acompañaba hay muchos informes que establecen que muchos aspectos de esa normativa tienen que ser modificados muchos términos vagos muchos términos y además muchos conceptos que dejan a regulación reglamentaria y yo desde luego

esta no toma en consideración porque vamos a votar en contra de la toma en consideración es una exigencia al gobierno y solo esperamos que el gobierno yo si le tengo que achacar que al gobierno del partido nacionalista vasco en su oposición debería de haber sido más específico podemos compartir algunas de las cuestiones que establece para oponerse a la tramitación del proyecto pero podía haber profundizado un poco más allá

pero esto es una exigencia una exigencia para que como decía no se parece que viene a ser una costumbre en esta cámara y es que las leyes de vivienda vengan in extremis porque nosotros volvemos a decir es necesario una ley de vivienda pero es que esta

sido objeto de una enmienda a la totalidad y en ese sentido es por lo que no vamos a votar en la toma en consideración nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

intentar desmontar una falacia que se está instalando en los últimos tiempos en esta cámara sobre y particularmente respecto al tema de la vivienda y yo no quería sacar el tema

en esta materia hay responsabilidad compartida de todos los grupos políticos seguramente

el grupo proponente y quien la va a apoyar bildu mire usted dieciseis años ha llevado el grupo bildu con responsabilidad en esta materia

y otros ocho con ezker batua señor matute dieciseis años

y doce años del grupo socialista doce años los últimos cuatro con apoyos del pp señora llanos no se me enfade pero ustedes apoyaron esta política de gobierno por lo tanto de las nueve legislaturas

ustedes han tenido responsabilidad en la inexistencia de una ley de vivienda responsabilidad directa ustedes no se han implicado seriamente en la resolución

eso que quede bien claro y para eso está la hemeroteca y miren ustedes los miembros que han formado parte del gobierno en los últimos veinticinco años y sale matemático clavado vamos a ver

pero yo no he dicho que haya que escuchar solo a los empresarios he dicho creo literalmente algo así como

por la materialización de una vivienda digna no sé qué entiende usted bajo esta expresión yo me estoy refiriendo a los grupos

de ese derecho del derecho constitucional a una vivienda de modo que he dicho alcanzar un acuerdo entre todos los que intervienen

o de un proyecto de ley es el camino para adoptar una decisión que luego será bueno o será mala el tiempo lo dirá

una decisión política previamente adoptada hacerlo de esta manera señorías constituirá sin duda y con toda seguridad una fuente de conflictos

algunas pruebas al respecto vamos a ver señor itxaso

rápidamente y tampoco me ha respondido por qué veinte días antes de presentar esa proposición de ley ustedes pedían que el gobierno elaborase

un anteproyecto de ley cada uno pues busca en esta materia las fotos y colocarse

y también respecto al grupo socialista decir que según nuestras informaciones los datos por los que se basa este proyecto de ley son absolutamente equivocados según los cálculos realizados por el anterior gobierno

para el año dos mil dieciséis tienen que ofrecerse al mercado seis mil cien viviendas en alquiler

y dos mil seiscientos setenta y cinco alojamientos nuevos

sin embargo los datos son otros señor itxaso en dos mil once se han construido setecientos viviendas frente a las mil quinientos y ciento diez alojamientos y en el dos mil doce

ciento once viviendas y noventa y uno alojamientos además debo recordarle que en las justificaciones que constan en el expediente que cuelga la página web del parlamento

para este periodo descansaban en un mecanismo muy conocido en esta cámara señor maeztu que era el de la colaboración público privada

la celebración de un contrato mixto para la concesión de cuatro mil viviendas en alquiler

y bueno pues decirle que en manifestación del propio

moztea proposatzen dut va a ser largo hora y media calculo si se consume todo el tiempo a ver a ver